dos iniciativas que tienen que ver con el sector comercial y con las que pretendemos traer a esta cámara la preocupación y las dificultades

que están viviendo los comerciantes el sector del pequeño comercio en nuestra comunidad

reclamando ayudas al gobierno vasco lo hacemos reclamando ayudas para las oficinas de dinamización del comercio en el primero caso y reclamando ayudas

con el desarrollo de la innovación y la excelencia en el sector de la distribución comercial las oficinas de dinamización comercial antes las denominábamos gabinetes de asistencia técnica al comercio

las últimas actualmente son promovidas en el marco de una orden

y se regulan las ayudas destinadas a ese efecto esas oficinas de dinamización representan en nuestra opinión un gran activo en la asistencia y en el apoyo a los comercios en nuestra comunidad así

y además demandado también por los propios agentes representantes del sector comercial como tratábamos de explicar en la justificación de nuestra propuesta creemos que aportan un asesoramiento eficaz y la destreza necesarios para el desempeño de la actividad vinculada

con la propia actividad de las asociaciones del sector labor que han venido desarrollando con proximidad

de todos los agentes implicados por lo tanto las ayudas nos parecen que son necesarias

de manera gratuita a los comerciantes teniendo en cuenta además que la mayoría son autónomos y tienen dificultades para acceder

de servicios de manera privada creo que esa colaboración pública privada es más necesaria que nunca hoy en día por eso

estamos hablando de planteamientos de sensibilización de difusión

en el ámbito comercial introducción de nuevas tecnologías o mejora y transformación de los instrumentos tecnológicos de los que disponen los comercios en nuestra comunidad

aquella que tiene que ver con la cooperación

urbanos especialmente o la que tiene que ver con la cooperación vertical aquella que nos habla de

de compras las que tiene que ver con las cadenas de distribución etcétera a esos se le añaden la introducción de estrategias sostenibles también

acciones que generen valor añadido

además hacia el pequeño comercio la actitud de su clientela en el segundo caso

a las ayudas destinadas al desarrollo de esa innovación y excelencia las actividades las políticas de formación que son promovidas en el marco en este caso de la orden del veintisiete

innovadora pionera fue destacada así en esta propia cámara por el consejero de

está dirigida al impulso de la competitividad del comercio en el país vasco a través de procesos

comercio excelente y que todos en esta cámara respaldamos son programas que requerían esfuerzo

creíamos que era oportuno poner en marcha en este caso dirigido a empresas del sector que ya habían iniciado procesos de certificación y que desean continuar

garantizar sus resultados que permitan mantener

a las empresas del sector para que puedan en este momento consolidar resultados y garantizar el empleo en el sector para todas estas ayudas por ello

que el gobierno y el departamento aclaren sus intenciones que

al sector que desde aquí podamos trasladar un mensaje cargado de certezas al pequeño comercio

de garantizar esas ayudas públicas al sector comercial la supervivencia

de dinamización la supervivencia de treinta y dos oficinas de dinamización comercial está en juego porque

el acceso a esas ayudas de no convocarse dentro del dos mil trece el programa de ayudas para esas oficinas pues seguramente muchas de las asociaciones de comerciantes que disponen hoy de esas oficinas

muchos de los ayuntamientos que disponen hoy también de esas oficinas para apoyar a su sector comercial local o comarcal

su continuidad por eso yo creo que es importante que sepamos que en este caso las ayudas el mantenimiento de los programas de ayudas del gobierno es fundamental para continuidad de esos programas y además es fundamental hacerlo

para garantizar además que se mantengan los compromisos presupuestarios que en dos mil doce

no dejar pasar este año en blanco sino garantizar que en el dos mil trece tengan acceso no solo que garanticemos el futuro de las oficinas de apoyo técnico al comercio sino que todos los programas que han

los que tienen que ver con el pequeño comercio han sufrido recortes graves en este año pues puedan seguir teniendo ese apoyo del gobierno de no convocarse este programa

muchas de esas oficinas están en riesgo además creo y así nos lo ha trasladado no solo a nuestro grupo sino al conjunto de los grupos

muchas asociaciones estarían abocadas prácticamente al cierre

en este caso la importancia que para el pequeño comerciante especialmente

tiene la acción y la colaboración y la información que reciben a través de sus propias asociaciones zonales patronales etcétera en el caso de la formación de las acciones divulgativas que era la segunda parte la segunda

en una se tratan de actividades de divulgación y de fomento de la innovación en un sector como decía que predominando los autónomos sin acceso

creemos que es vital que el gobierno también mantenga este

atomizado que en este momento necesita especial atención en el ámbito de la formación y de la puesta en marcha y del mantenimiento no puesta en marcha en el mantenimiento de los programas de acción divulgativa por eso creemos

promover la calidad en el comercio exige en este momento al gobierno también en este campo no solo en el primero poner en marcha

ordenes las convocatorias que permitan las resoluciones que permitan poner en marcha las convocatorias que posibiliten las ayudas dentro del dos mil trece entendemos que su interés público es obvio y por eso hemos presentado estas propuestas

es importante que hayamos llegado a un acuerdo con el partido socialista para presentar una enmienda de transacción que recoge estas reclamaciones en el ámbito de la dinamización comercial y en el ámbito de la innovación y que además incorpora

ese compromiso para buscar que todos esos programas que tienen que ver con la sensibilización y la promoción y la innovación en el comercio se pongan en marcha que no

también en este caso de las dificultades económicas por las que atravesamos y que además

un especial hincapié en que el objetivo tiene que seguir siendo los planes para fomentar el empleo también en el sector de la distribución comercial

el pasado viernes el grupo parlamentario socialista interpeló al lehendakari sobre cuáles eran los propósitos del gobierno vasco con relación al desarrollo de políticas

instando al gobierno a convocar urgentemente y con la misma dotación presupuestaria que en el año dos mil doce las ayudas destinadas a las oficinas de dinamización para el comercio y al desarrollo de la innovación y la excelencia en el sector de la distribución comercial instamos a afrontar las necesidades de modernización de los establecimientos comerciales y a incentivar estrategias zonales de cooperación dinamización

y a fomentar el empleo en este sector los socialistas exigimos hoy con esta propuesta transada

al acuerdo firmado entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco y que el propio lehendakari urkullu sancionó con su firma para una euskadi

queremos que este acuerdo llegue al comercio vasco y por eso exigimos hoy el cumplimiento sin dilación

y empleo se refiere cuando acordamos en ese pacto crear un programa específico y concreto de apoyo a la economía de proximidad dirigido al sector terciario y fundamentalmente al comercio al turismo y a la hosteleria

y transmisión empresarial así como de revitalización del comercio en los centros urbanos y exigimos los socialistas que se desbloqueen de una vez las ayudas al comercio porque no hay más que ver que otra política comercial es posible como la que se aplicó

que dio buenos resultados en un momento especialmente complicado para el consumo y con una crisis económica

se consiguió la pasada legislatura que el empleo en el comercio minorista creciera más de un cuatro por ciento

y además se pusieron en marcha programas y acciones para la defensa y potenciación del sector comercial y resulta muy poco coherente que el gobierno vasco y la generalitat

para defender un modelo comercial propio a través de esa llamada declaración de barcelona abogando por el comercio de proximidad y el equilibrio entre

aquí en euskadi sea el propio gobierno vasco el que a su comercio de proximidad a la hora de la verdad le imponga recortes en las ayudas y drásticos ajustes tratándole además al sector comercial de manera injusta con engaños en convocatorias en el último trimestre para que estas sean concedidas a fin de año en el mejor de los casos y ganando tiempo de forma tramposa en la ejecución presupuestaria porque desde el mes de enero se podían haber convocado esas ayudas públicas

dos mil trece y con la declaración de barcelona el gobierno vasco ha intentado señalar con el dedo al gobierno de rajoy como el único responsable

y de provocar la desertización de pueblos y ciudades corriendo un tupido velo sobre la gestión que a lo largo de este año dos mil trece que ha realizado el propio gobierno vasco

vasco aplicando en el ámbito de las competencias que nos son propias la supresión la reducción y el recorte en las ayudas al comercio y por tanto el gobierno vasco a lo largo de este año dos mil trece lo que ha puesto en valor en ese dicho de tanto monta monta tanto

que ponga el mismo énfasis en la gestión de la aplicación de las ayudas al comercio vasco que el que ha puesto en la defensa competencial propia y le pedimos que deje de poner en peligro la supervivencia del comercio de euskadi

sin tener una estrategia de choque el comercio minorista

es una fuente tradicional de la creación de empleo en el país vasco el pasado año el comercio aportó el once treinta y tres por ciento del producto interior bruto genera y sostiene el catorce por ciento del empleo en euskadi

que son los que corresponden al comercio minorista está integrando el sector a cuarenta y cinco mil empresas de distribución

minorista y si bien el comercio constituye un eje fundamental del tejido productivo vasco tal y como avalan estas cifras también es un sector frecuentemente olvidado por las administraciones públicas por eso apoyamos hoy esta propuesta transada

a lo largo de la legislatura pasada porque nos preocupa y mucho la consolidación

en la que se encuentra el comercio minorista en euskadi una situación que además viene siendo denunciada

desde principios de año de este dos mil trece unos datos que marcan una caída de ventas del comercio minorista en euskadi del ocho por ciento en el mes de agosto

una caída del quince coma cinco por ciento respecto al pasado mes de julio

de ventas respecto al estado respecto a españa que tiene una media del cuatro coma dos por ciento llevamos un acumulado

y para más inri para pasarlo peor el tema del desempleo

ha crecido en seiscientos sesenta y nueve personas en el sector comercial el segundo sector de todos los sectores económicos que tiene euskadi que ha crecido más en desempleo y los presupuestos que el lehendakari

cámara representaban en su momento una reducción presupuestaria

debe tener el gobierno en la generación de riqueza en euskadi el gobierno vasco renunciaba con esos presupuestos a una política que supusiera un estímulo económico

en políticas de empleo renunciaba a las ayudas a las empresas renunciaba a las ayudas al comercio y en el caso que nos ocupa es bien visible el hecho de que

los presupuestos destinados a comercio interior un ochenta y dos coma doce por ciento respecto a los del año dos mil doce y los presupuestos de desarrollo y competitividad se recortaban un veinticinco por ciento con respecto al año dos mil doce

no haber podido responder a determinadas subvenciones en el ámbito de promoción comercial y marcó la necesidad de una reflexión profunda en la atención institucional

a los comerciantes angustiados por el futuro de sus negocios y por el futuro de sus empleos no les vale esa estrategia de pedir tiempo muerto a los agentes del sector

no vale a euskal dendak no les vale a las plataformas de comercio urbano no vale a las asociaciones de comerciantes

y lo dije el viernes pasado y además lo repito porque además creo en ello el gobierno vasco tiene que pasar de una vez del dicho al hecho el gobierno vasco no puede poner más excusas y hay que potenciar de verdad el comercio minorista no solo con palabras

sino con hechos con partidas presupuestarias suficientes

al sector comercial por lo que supone para el tejido productivo vasco y tiene que darle la prioridad que merece y que se ha ganado el sector comercial por lo que representa en el presente y va a representar en el futuro de la economía vasca

de esa euskadi moderna solidaria sostenible y competitiva muchas gracias eskerrik asko

baita ere murrizketak aplikatuak izan dira los cuatro ejes fundamentales teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos

de comercio en la materia para estimular y que yo creo que demuestran y muestran nuestro compromiso con el sector comercial

además repensadas porque nos encontramos en otros momentos tienen cuatro ejes fundamentales que son el conocimiento y personas la empresa el territorio y el marco institucional toda una serie de acuerdos con toda serie de instituciones por dar datos en lo que se refiere

se ha puesto y se ha desarrollado se ha puesto en funcionamiento el dispositivo de observación ikusmer

euros hay también becas de formación

las oficinas de dinamización que luego explicaré por qué la convocatoria se realiza en estos momentos

y también un servicio de coordinación de las oficinas de dinamización precisamente

en el ámbito de la empresa por encima

se puso en marcha una línea de apoyo financiero del gobierno vasco global para todo el conjunto de las empresas que estaba dotada trescientos millónes de euros de los cuales veinte millónes se dedicaban específicamente al comercio desde ese punto de vista todas las peticiones de financiación que han llegado al gobierno vasco han sido atendidas además de todo eso

modernización de los establecimientos comerciales con una dotación de dos coma nueve millónes de euros existen y han existido también planes renove

en el ámbito de las ventanas dotado también con uno coma tres millónes de euros o las calderas domésticas

euros en el ámbito de la cooperación interempresarial

con euskomer y también con euskal dendak en lo que se refiere al

también se ha aplicado el programa de la dinamización de los entornos comerciales urbanos con una dotación de uno coma tres millónes de euros y luego desde el punto de vista institucional

y se han puesto en marcha acuerdos con las gerencias de comercio

de una financiación y luego otra suplementaria con lo cual yo creo que muestra a las claras un conjunto de medidas que si bien

evidentemente muestra cuál es el compromiso de este gobierno con el sector comercial

debe de repensar cuáles son las políticas públicas para precisamente beneficiarlo también existe un plan de adaptación o una especie de plan estratégico que evidentemente como líneas maestras dispone por un lado la mejora de la competitividad por otro lado impulso a la actividad comercial

del marco institucional y de gestión como todos ustedes saben producto de toda una serie de negociaciones con el gobierno central el gobierno vasco

una relajación del déficit a resultas de lo cual de toda la cifra global tres millónes se han dedicado al sector comercial lo cual

cuál es la sensibilidad que tiene este gobierno con el sector desde ese punto de vista con esos tres millónes se ha dotado a las oficinas de dinamización comercial se ha dotado también de un presupuesto suplementario a los entornos comerciales también se ha dotado con financiación suplementaria para el programa

de las zonas de gran influencia turística para la modificación de la ley aspecto que yo creo que es importante y por lo tanto toda una serie de actuaciones que

que hemos obtenido en relación a la enmienda parecería por las palabras de la señora corcuera que nosotros íbamos a votar en contra pues

podría llevar a pensar a más de uno que nosotros íbamos a rechazar completamente la enmienda transaccional presentada no es el caso porque hemos estado muy cerca del acuerdo

votar a favor si los proponentes acceden a que se vote

y lo vamos a hacer porque evidentemente nosotros estamos de acuerdo con esa medida y no solo estamos de acuerdo sino que la vamos a aplicar

pues sencillamente porque ha sido ahora cuando hemos obtenido

a ese programa y poder dotar a esas oficinas por lo tanto cuando va a salir dentro de un par de semanas o tres máximo la orden de convocatoria y esa partida se va a ejecutar este año satisfaciendo así las necesidades de las oficinas de dinamización que coincidiendo con el señor

relevante para el sector comercial no así en lo que se refiere al programa de la excelencia y no es porque no haya voluntad sino que simplemente porque desde el punto de vista práctico

aplicar el programa de innovación y de excelencia bueno yo creo que el partido socialista que anteriormente también pero en los últimos tres años y medio ha estado al frente del gobierno vasco en solitario además

o intentar atender a lo que son los nuevos procesos administrativos

que esto no se hace de la noche a la mañana y en concreto en el programa de excelencia si nosotros publicáramos mañana la

para hablar genéricamente nos pasaríamos o nos llevaría hasta el mes de febrero del año que viene la resolución definitiva de las subvenciones a otorgar con lo cual nos saltamos de ejercicio presupuestario y sería imposible poder aplicarlo es de hecho absolutamenteimposible el poder aplicarlo

existirá un programa en el ámbito de la innovación y de la excelencia que responderá

y que evidentemente lo van a finalizar para obtener ese tipo de certificaciones pero el año dos mil trece es materialmente imposible aplicar el programa de innovación y excelencia es imposible y por eso votaremos en contra y para finalizar en lo que se refiere al último punto de la transacción nosotros estamos plenamente de acuerdo y lógicamente votaremos a favor si tiene a bien los proponentes el que se pueda votar

gracias presidenta vamos a ver señor

comenzaba su intervención diciendo que o al menos el traductor si no lo habrá traducido bien pero hablaba de datos manipulados cuáles

entonces no es cierto que haya caído el comercio un ocho por ciento en el mes de agosto en la interanual no es cierto que haya

del año dos mil trece no es cierto que llevemos entonces un descenso

se manipulan los datos de ese instituto pues podemos coger otros porque supongo que el observatorio del comercio

esto de manipular los datos me resulta un poco extraño oído así

en seiscientos sesenta y nueve personas en el comercio minorista es un dato objetivo que no le gustará que le enfadará seguramente como a mí pero oiga que es que es objetivo

que están en las estadísticas tiene usted la página web si no se la dejo luego vamos a ver

de que el programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de cooperación dinamización y competitividad urbana en el dos mil doce tuvo una dotación de cinco millónes trescientos cincuenta y siete mil euros y en el año dos mil trece de bostehun eta laurogeita hamabi mila se han desviado algún cero ha corrido algún cero y no nos hemos enterado eso es demagogia

destinadas a la innovación y a la excelencia en el sector de distribución comercial es al que usted le pone tantas pegas porque no da tiempo me quiere decir que no puede usted hacer la convocatoria como se hizo en el año dos mil doce en el mes de marzo

porque no estaban dispuestos a invertir y a apoyar el comercio minorista en euskadi porque no era su prioridad no era la prioridad del gobierno vasco y hemos tenido que llegar los socialistas al pacto con el partido nacionalista vasco para hacer que consten en ese pacto

le guste o no le guste esa es la realidad la pura realidad le voy a decir más en el apoyo a la modernización de establecimientos comerciales en el año dos mil doce

y la demagogia que hace esta parlamentaria puso una dotación presupuestaria de cuatro millónes seiscientos cuarenta y cuatro mil euros novecientos mil ha puesto este gobierno

ligera diferencia en demagogia y sigo

mire señor uribe etxebarria el comercio vasco es un sector económico que en los últimos tiempos no es que lo esté pasando mal es que lo está pasando

y por eso pedimos que este gobierno vasco rectifique su política de austeridad y de recortes y que deje de hacer una política equivocada que ha afectado profundamente vasco los socialistas exigimos a este gobierno que no eluda sus responsabilidades ante el comercio minorista en euskadi que deje de apelar a enemigos externos

porque eso está ocurriendo con este gobierno que ahora nos dice desde barcelona que es exclusivamente el gobierno central

y es el gobierno central el que destruye puestos de trabajo en el sector comercial una afirmación que está eludiendo la responsabilidad que tiene el gobierno vasco para con el comercio vasco

con una reducción del ochenta y dos coma dieciséis en el comercio interior y eso no son datos manipulados y eso no es demagogia eso consta en los presupuestos que ustedes presentaron y la acción política es clave en este sector porque lo que hizo el gobierno del lehendakari patxi lópez

eso es la realidad por eso pedimos rectificación de política y que haga un especial esfuerzo en el comercio minorista y por la creación de empleo en ese sector porque los que padecen día a día la crisis y esta coyuntura y les está golpeando en la cara son las asociaciones de comerciantes las entidades de comerciantes las plataformas de comercio urbano esos son los que día a día están sufriendo

y ante esos señores y ante esas plataformas y entidades hay que dar respuesta no vale decir yo voy a reflexionar sobre el asunto hay que darles una respuesta contundente y un plan de choque y ese no es ese plan de acción de cuatro ejes

si no que además le hablaba de demagogia y me reafirmo plenamente en ello hablo de datos manipulados porque usted evidentemente utiliza los datos

en un futuro próximo pero evidentemente los datos que usted utiliza los manipula porque usted no hace

mínimamente temporal para analizar cuál es la evolución y sabe cuál es la diferencia de este gobierno en relación en lo que se refiere al presupuesto de este año en relación al anterior

y que los recortes los recortes en el sector comercial

y los recortes en el sector comercial no se han producido por primera vez en el año dos mil trece si no que en el anterior gobierno

y dejemos de engañar a la ciudadanía recortes los aplicamos todos el gobierno anterior también aplicó recortes también los aplicó por lo tanto datos yo estoy dispuesto a analizarlos con usted

cojámoslos en una serie temporal para analizar mínimamente la evolución insisto también

a las magnitudes de ventas y luego también al empleo en el sector comercial

trece que ocurre y efectivamente yo creo que las políticas que puedan desarrollar las administraciones públicas en favor del comercio

pero mire yo le voy a destacar tres aspectos que los propios comerciantes no sé si a usted pero bueno a nosotros nos trasladan y que son también fundamentales a la hora de analizar cómo va el sector comercial y a la hora de

la primera es la confianza del consumidor a mí comerciantes me dicen mira luke delante de mi escaparte pasan toda una serie de personas que siguen cobrando

lo que ocurre es que hace cinco o diez años en mi comercio

y ahora por la incertidumbre que existe por la falta de confianza de los consumidores por la incertidumbre por si van a perder su empleo entran cero coma tres veces al mes la confianza segundo nosotros me dicen somos bastante dependientes también del sector industrial y creo que la representante de eh bildu

el sector comercial minorista de distribución va a ir bien y en tercer lugar es una de las líneas que se están desarrollando y que yo creo que hay que profundizar evidentemente si usted analiza tanto al comercio como a la hosteleria qué es lo que entre comillas ha salvado y igual puede ser exagerada esa palabra y ese término lo reconozco ha sido el turismo

el turismo de comercio el turismo de moda o llámese como usted quiera llamarlo pero bueno esas tres líneas y esos tres aspectos también

y evidentemente el gobierno vasco ante una situación tremendamente complicada y que

los viejos parámetros no sirven no solo está repensando sino que también está actuando es decir está actuando porque usted da aquí la impresión como que nosotros estamos parados y no se ha dispuesto de la financiación adecuada e inmediatamente

administrativos que toda persona responsable en cualquier administración debe de cumplir ustedes también en el gobierno vasco en la anterior legislatura se han puesto en marcha

a finales de octubre se va a publicar la orden de convocatoria

desbloquear esa financiación y en relación a la excelencia que no me han dicho yo simplemente reiterar que resulta administrativamente imposible poder aplicar el programa de innovación y de excelencia este año

no me han dicho nada al contrario señor oyarzabal yo le reitero que tengo el calendario

y por tanto completamente inviable para poder aplicar el año dos mil catorce sí que habrá un programa en ese ámbito y para terminar pediría si ustedes tienen a bien la votación por separado de los puntos uno y tres por un lado

paso a defender una moción que surge como consecuencia de la interpelación realizada en este parlamento allá por el mes de junio y que propone básicamente dos cosas distintas aunque

son dos cosas diferentes y que por lo tanto podrían incluso votarse de manera separada si ustedes así lo

el primero de los puntos lo que propone básicamente se que el cálculo del cupo vasco

transparente y de manera solidaria creo que ningún demócrata y desde luego nadie que crea en la igualdad puede votar en contra de esta primera

de upyd lo que proponemos en el primer punto de la moción es que el cupo vasco se calcule de manera correcta transparente y solidaria y en el segundo de los puntos lo que hacemos es presentar nuestro modelo de reforma del estado autonómico es una propuesta de upyd que obviamente puede ser criticable y que puede ser debatida y que puede ser puesta en cuestión

lugar a dudas se trata de garantizar la máxima igualdad ciudadana la máxima igualdad fiscal y por lo tanto ya digo cualquier demócrata en esta cámara entiendo que no podría votar en contra del primero de los puntos ya digo por lo tanto el primero de los puntos lo que proponemos es que este parlamento inste al gobierno vasco a promover una aplicación correcta y transparente del sistema de concierto económico siguiendo los principios

que dice que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso

y en el artículo ciento treinta y nueve punto uno que dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del estado y para ello en primer lugar lo que proponemos es que se procederá al cálculo correcto transparente y solidario del cupo vasco de modo que se valoren correctamente las competencias estatales no trasferidas y se incluya

de todos los instrumentos de solidaridad interterritorial y en segundo lugar se revisarán con la máxima transparencia los parámetros de los impuestos indirectos y especialmente los ajustes por iva de tal forma que euskadi

de su consumo real por lo tanto lo que hacemos en este primer punto de la moción es defender la igualdad ciudadana la igualdad fiscal y la ausencia de privilegios nosotros no compartimos el sistema de concierto económico pero

se realice de manera correcta entiendo que puede ser legítimo defender el sistema

es constitucional pero lo que nosotros décimos es si se mantiene

al menos que el cálculo del cupo se calcule bien se lleve bien a cabo que no haya sobre financiación que no haya privilegios que no haya desigualdad que se garantice la igualdad ciudadana y la igual fiscal es decir lo que defendería cualquier

lo que planteamos es la propuesta que upyd defiende para la reforma del estado autonómico insisto este segundo punto puede ser más discutible

de upyd nosotros lo que proponemos es que este parlamento inste al congreso de los diputados a impulsar todas las formas legales y constitucionales que sean necesarias para promover

simétrico y cooperativo un estado federal conformado por comunidades autónomas todas ellas con las mismas competencias se cierre la distribución de competencias entre estado las comunidades autónomas y los entes locales que asuma el estado una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias clave

de todos los ciudadanos y se suprima la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales esto es lo que en opinión de upyd interesa al conjunto de los ciudadanos y es una propuesta que no tiene como objetivo

a los nacionalistas ni tampoco se propone esta reforma del estado autonómico para contentar

es absolutamente imposible porque como saben todos ustedes son absolutamente insaciables es una propuesta que tiene como objetivo por lo tanto reformar autonómico y defender el interés general de la mayoría de los ciudadanos entiendo por lo tanto que aquellos partidos políticos que defienden

deberían votar a favor al menos del primero de los puntos que incluye la moción

foral de financiación es objeto de creciente controversia el debate se puede decir que está abierto y que es incluso

y es imparable como ustedes saben perfectamente upyd es muy crítico con el sistema desde el primer pleno en el que tuvimos oportunidad de intervenir

allá por el mes de marzo del año dos mil nueve trajimos el asunto a este parlamento de manera clara directa y sin disimulos

está actualmente configurado y tal y como se realiza el cálculo del cupo

nuestra aportación al estado no respeta los principios de igualdad progresividad y solidaridad establecidos por la constitución española por cierto fin de la cita porque esta no es una frase

por un miembro destacado del partido socialista allá por el año dos mil cinco nuestra aportación al estado no respeta los principios de igualdad

establecidos por la constitución española nosotros creemos en la igualdad y criticamos todos los privilegios incluso cuando esos privilegios

ni hemos sido los primeros en denunciar este hecho ni tampoco los únicos podría ofrecerles

listado de economistas intelectuales y representantes políticos que inciden en esta cuestión por cierto

están aquí presentes con lo cual pido que ninguno de ustedes abandone la sala para que pueda escuchar lo que

en los últimos tiempos porque es ciertamente interesante lo que algunos de ustedes han dicho observo que uno de ellos

a la sala insisto porque son varios de varios partidos políticos sí que es cierto que somos el primer partido vasco que lo ha hecho criticar de esta forma abierta el sistema de concierto económico pero en todo caso

estudios y declaraciones ciertamente interesantes ya en dos mil cinco un miembro del comité nacional del partido socialista de euskadi con motivo del veinticinco aniversario del concierto económico afirmaba lo siguiente y está escrito los socialistas vascos tenemos la oportunidad

una modificación del concierto económico para hacerlo solidario con el resto de españa nuestra aportación al estado decía no respeta los principios de igualdad progresividad y solidaridad establecidos por la constitución española

los socialistas vascos tenemos que preguntarnos si queremos ejercer realmente el socialismo siguiendo los principios según los cuales se fundó el partido político más antiguo

un miembro del comité nacional del partido socialista de euskadi

es objeto de creciente controversia en fin no digo quién escribió eso porque no está presente pero lo puedo decir después en el turno de réplica ahí están los artículos y estudios realizados por distintos intelectuales y técnicos independientes que saben del asunto y que son capaces de hablar con absoluta ángel de la fuente o carlos monasterio y artículos de

javier tajadura josé maría ruiz soroa francés de carreras

y distintos representantes políticos ya digo aquí presentes algunos

el propio consejero de hacienda de la comunidad de madrid que de momento no es de upyd se preguntaba hace unos meses si tiene sentido que las comunidades más ricas

ya digo un consejero del partido popular los socialistas andaluces

afirmaron en relación a este debate que ninguna comunidad autónoma debe ser excluida de la solidaridad porque es mandato de la constitución

pidió hace tres meses la eliminación del concierto económico decía si queremos una financiación justa empecemos por eliminar de la constitución los privilegios que hoy existen

no pretendía defender la igualdad sino que lo que básicamente hacía era tratar de apropiarse

un trato privilegiado por parte de los restantes ciudadanos españoles pero ahí está la afirmación y por cierto de distintos representantes políticos el líder de los socialistas navarros mostró su deseo de ser solidario con el resto del país pero respetando nuestra singularidad

que han dado su opinión sobre la materia yo les escucho muy bien a ustedes les escucho atentamente allá donde voy y siempre llevo una libreta donde apunto cosas que ustedes dicen para luego poder utilizarlas en este tipo de debates el propio

afirmaba en junio de este año el concierto económico no está en cuestión pero hay que abordar una financiación solidaria

en nuestro primer punto nosotros cuestionamos el concierto económico puede no cuestionarse es legítimo es respetable eso sí hay que abordar una financiación solidaria estoy de acuerdo con esas palabras por tanto del señor lópez en fin ustedes lo saben perfectamente bien el concierto económico vasco y el cálculo del cupo

muy superiores a los observados en cualquier comunidad de régimen común tal hecho reconocido por unos y por otros significa que los ciudadanos vascos podemos ser considerados como ciudadanos privilegiados respecto a los restantes ciudadanos españoles lo cual no puede ser aceptado al menos por aquellos partidos políticos que se consideren progresistas y se consideren defensores de la igualdad

los ciudadanos tal como se ha implementado en la práctica el sistema de concierto genera una enorme asimetría financiera entre los territorios forales y el resto lo que supone

del principio de igualdad recogido en distintos artículos de la constitución española

en esa moción todo el mundo sabe que el concierto económico

para los ciudadanos vascos y todo el mundo sabe que es contradictorio decir

en el conjunto de europa y mantener sin embargo en españa cinco regímenes fiscales diferentes o en euskadi tres políticas fiscales diferentes con las disfunciones por cierto que ello provoca en duplicidades ineficiencias o fraude fiscal todos los representantes políticos que

y con cara de pena salen al paso y protestan ante el hecho de que haya quien diga que el concierto económico es un privilegio bien sea dentro de euskadi o fuera de euskadi

la hemeroteca es ya bastante voluminosa el actual portavoz socialista en el parlamento vasco dijo antes de abrirse la polémica que gracias al concierto económico los vascos no pagamos no pagamos nada al resto de los españoles

el señor maroto alcalde de vitoria afirmó en la campaña electoral vasca sentado a medio metro

cuando se le preguntó qué opinaba en relación a la independencia respondía lo siguiente soy un hombre pragmático no nos interesa la independencia ya tenemos

nosotros somos progresistas defendemos la igualdad criticamos y censuramos todos los privilegios por lo tanto la pregunta es creemos en la igualdad o no creemos en la igualdad nosotros creemos en la igualdad y de hecho

que a los vascos nos interesa la igualdad ha habido quien ha dicho que estas críticas le provocan dolor lo realmente doloroso en nuestra opinión

defienda privilegios para unos ciudadanos frente a los restantes en definitiva

y con todo el ánimo constructivo del mundo proponemos con el primer punto de la moción irrechazable insisto para cualquiera que se considere demócrata

se realice de manera correcta que el sistema sea justo y que no provoque desigualdad esto es lo que básicamente pedimos en el primer punto

porque se sabe que sería inviable y que la introducción de un concierto económico en cataluña supondría una quiebra adicional en el principio de igualdad por eso se les dice que no

porque sumaría más de cien porque es imposible por lo tanto

esto es lo que nosotros defendemos insisto primer punto

una aplicación correcta y transparente del sistema de concierto económico mientras el sistema exista punto número dos plasmamos

nuestra reforma del estado autonómico el modelo que upyd defiende para el conjunto del estado el punto dos de la moción es una propuesta

que puede dar lugar a que los grupos voten en contra porque no comparten ese modelo que upyd defiende en nuestra opinión el punto uno nadie ningún demócrata nadie que crea en la igualdad podría rechazarlo por lo tanto

el voto favorable al conjunto de la moción pero principalmente y sobre todo a favor del punto número uno de la moción gracias eskerrik asko maneiro jauna

señora presidenta señorías señor maneiro

con los que me ha convencido que los trae a peso por cantidad y no por calidad porque hoy tenía usted una oportunidad no buscada pero que se le ha cruzado en el camino

establecen unilateralmente una fijación de cupo casi el doble de la que actualmente tenemos

pero usted en la necesidad que tiene de agotar los tiempos ha hecho más bien una recopilación de hemeroteca y está bien las citas del pasado y está bien todo lo que usted quiera traer como argumento de apoyo a un debate pero está mucho mejor que usted fuera capaz de plantear algún debate fresco razonable del momento que realmente esté en la agenda política que realmente tenga

algo que en su larga y reiterada e insistente intervención porque ha dicho veinte veces insisto no ha podido hacer bien

luego usted como siempre haga lo que le dé la gana pero como reflexionar es gratis

mediante la decisión del voto sino simplemente mediante una posición intelectual

algunas reflexiones la primera es la oportunidad

aquí mire cuando los nacionalistas hablan de un nuevo estatus jurídico hablan de un nuevo marco político jurídico es frecuente escucharle a usted que esa es una función política de tensionamiento de unilateralidad que

unas normas tenemos un planteamiento de organización y de funcionamiento político y jurídico y que

a tenor de ese planteamiento con el marco en el que vivimos en primer lugar el concierto económico es parte del sistema constitucional y es un sistema constitucional pactado y es pactado en sus contenidos y también en sus procedimientos y usted

porque no ha sido capaz de explicarlo aquí y de demostrarlo le tacha al concierto y al cupo

de insolidario oiga hasta donde yo sé no sé hasta donde usted sabe pero hasta donde yo sé el concierto económico un instrumento económico financiero de este autogobierno del país vasco que ha sido acordado y pactado constitucionalmente

cómo se tiene que proceder a la revisión del cupo

o del tipo que sea de lo que establece la normativa del propio concierto por lo tanto me extraña de entrada y es una reflexión muy en serio que le propongo

que tiene la capacidad de actuar en el país vasco por este autogobierno y por estas normas y estos instrumentos

institucionales y pactados sin más y sin ninguna explicación sin ninguna documentación sea capaz de denostar de esta manera

también le ayudan a usted a ser parlamentario y a actuar como parlamentario en esta institución

planteamientos políticos planteamientos económicos planteamientos sociales que serían inviables en una autonomía de carácter común porque efectivamente nosotros tenemos

que es propio que es singular que es producto de cómo se organiza este país y que efectivamente se puede modificar cuando haya condiciones para ello pero no parece que las mejores condiciones sean las del peso es decir las iniciativas a peso la de la matraca de upyd permanentemente

precisamente en ese aspecto en el aspecto de estar de acuerdo

el resto de los parlamentarios y parlamentarias es una insistencia un poco absurda porque si tuviese algún valor si tuviese algún elemento de contraste

reflexionar pues igual tendría alguna razón pero querer hablar mal gratuitamente del cupo del concierto del autogobierno

desde una posición tan minoritaria en realidad no sé a qué obedece

sino el de buscar los recovecos por donde sea para llevar la contraria a todo el mundo y así

entiendo que puede ser complicado para un partido tan joven y con una amalgama tan rara de ciudadanos y ciudadanas escoger una ideología y escoger un programa y por eso bueno parece que está más a lo que cree que puede ser flancos o elementos

consistentes de los demás o al oportunismo o al populismo que la propia sociedad o sectores de la sociedad le pueden ofrecer pero la verdad que eso ningún valor político yo se lo quiero trasladar así porque si a usted le parece pues reflexionamos ya que nos obliga a venir aquí

recurrente y permanente como es este pues bueno pues ya reflexionemos un poquito a ver si podemos encontrar algunos otros horizontes mire yo creo que en estos momentos el concierto tiene una salud extraordinaria si quiere ya que coge la hemeroteca no vaya a opiniones particulares personales que además están hechas cada una en su contexto y que me daría exactamente igual las que usted coja

vayamos a hechos a hechos realmente importantes como se merece un debate del concierto económico y como se merece un debate del autogobierno oiga si usted echa la mirada hacia atrás verá que había muchos partidos que renegaron de la autonomía que luego se integraron en la autonomía

otros que lo mataban y hoy estamos todos juntos dentro del concierto y

del autogobierno podrá ser con planteamientos

y con horizontes distintos pero no cabe duda de que tenemos ahí un planteamiento que es fuerte que es común y no sé me parece que esto también

lo debiera de tener en cuenta para no tensionar innecesariamente entiéndame bien lo de tensionar porque es muy difícil que tensione pero vamos un poco

total en el congreso de los diputados porque este asunto se ha llevado y ya se ha llevado si allí le dicen que no y aquí también que no oiga no nos dé la tarde es que claro en todos los sitios le dicen que no y usted erre que erre como julita la de la petaca venga a darnos

también de vez en cuando traer algunas cosas de valor de calidad no es necesario que todo sea de cantidad pero le voy a decir alguna cosa más

como nadie buena cuna tiene porque para eso se formo en el partido socialista usted que dice que

oiga para qué quiere usted que tenga más dinero el gobierno de españa que cree que va a hacer con el dinero le parece poco lo que está haciendo con lo que tiene

le quiere financiar más ajustes le quiere financiar más reformas laborales

menos dinero para la sanidad más copagos farmacéuticos el qué claro es que además claro usted no tiene ni tan siquiera el don de la oportunidad siempre llega cuando ya solo queda humo en la cocina oiga un poquito antes y podrá probar un poquito claro es que en estos momentos con la política que está haciendo tan desastrosa y tan conservadora el partido popular

la catalana va y dice se me ha ocurrido bueno la que le cayó la del pulpo en fin

cierto don de la oportunidad mire solidaridad usted habla de solidaridad hombre la solidaridad es algo que nosotros expresamos se puede expresar de muchas maneras no es necesario que los recursos que da el concierto y la capacidad de autogobierno se tengan ahora que repartir

porque hay una política más social sabe por qué se hace más solidaridad aquí con nuestro concierto y con nuestro autogobierno

porque utilizamos los recursos para hacer políticas sociales

para hacer una reforma fiscal para que paguen más algunos que pueden pagar más y para que podamos financiar la sanidad la educación y complementar esos presupuestos

y que ahora se le va a dotar de más posibilidades eso es solidaridad eso es utilizar el concierto

para las personas y usted lo que plantea es no no démoselo a rajoy no sé si en lo que está planteando en el proyecto de presupuestos

haga más recortes en fin señor maneiro yo creo que es una

eso le viene bien a usted a mí no porque sino le diría algunas cosas más pero yo creo que es una deslealtad profunda ser un parlamentario vasco y tener sentido de país vasco tan poco cariño por los instrumentos políticos del país vasco

y a los instrumentos que tenemos de autogobierno yo creo que lo debiera de revisar es una sugerencia seguro

el cupo no depende de la mejor o de la peor gestión de las haciendas vascas

es decir de sus cargas generales no asumidas y aun cuando la recaudación de todas las haciendas vascas fuera inferior a sus necesidades se verían obligadas

señor maneiro quiere sembrar el desconcierto atacando al concierto hablando de privilegios y recálculo ustedes pescar votos en otros caladeros denostando el concierto económico tal vez le resulte pero se confunden y hacen mucho mal a euskadi llámenle privilegio otros le llaman conciertillo

seguirá defendiéndolo para que cada vez sea mejor y más útil para nuestro grupo parlamentario para eusko alderdi jeltzaleak pnv es un oportunidad para recordar nuestro ser estar somos una nación en europa el pnv lo tiene claro ese es

una nación con cultura propia con idioma propio con historia compartida con derecho propio

con acierto y con eficiencia y sobre todo con proximidad con cercanía a las personas a su realidad a sus necesidades y a sus demandas

han hecho de este instrumento tenemos hoy el modelo vasco de protección social la sanidad el sistema educativo la red de comunicaciones por ponerle un ejemplo

todo ello se debe en gran medida a las competencias que tenemos asumidas y al concierto económico que dota a euskadi de estructura de estado

en euskadi regulamos nuestro sistema tributario recaudamos nuestros impuestos y en euskadi decidimos dónde y en qué gastar aquí

no es constitucional como decía usted es preconstitucional nadie nos ha concedido nada en ningún caso es un privilegio es una singularidad de los territorios forales vascos de araba de bizkaia de gipuzkoa y de navarra en el caso del convenio con un fundamento histórico

y respeta la constitución porque existía de antes preconstitucional

y la participación del país vasco en las cargas generales del estado habla de políticas fiscales en europa

y el convenio casualidad es esto lo que se está defendiendo zuzenbide arautuan berezienetakoa da indarrean dauden federalismo fiskalaren

y el estado acuerdo entre las partes esa es la esencia la naturaleza del concierto económico bilateralidad entre iguales esa es la regla del juego

está montado de tal forma que si nos caemos españa no viene a rescatarnos se trata de un modelo de riesgo

hacía dentro entre las instituciones vascas dependiendo de nuestra propia política tributaria lograremos mayor o menor financiación tendremos o no suficiencia para financiar las políticas públicas a veces

no tanto pero asumimos el riesgo llevamos treinta y tres años asumiéndolo habla maneiro de sobre financiación de sobre financiados nada euskadi supone el seis coma veintiuno por ciento sobre el producto interior bruto de la economía española somos el cuatro coma sesenta y siete por ciento más o menos del total de la población del estado y sin embargo

índice de imputación es del seis coma veinticuatro por ciento díganos si euskadi y navarra no somos aportantes netos quién lo es señor maneiro

melilla extremadura murcia castilla la mancha ellos son aportantes netos ellos cuando dice que estamos sobre financiados se refiere que ellos son los que nos están financiando de verdad señor maneiro

el tribunal supremo de españa ha dictado ocho sentencias en dos mil doce donde se dice que no hay conculcación del principio de igualdad no hay del principio de solidaridad y tampoco

a que no tiene que haber privilegios para territorios de comunidades autónomas kupoaren berkalkulaketari dagokionez

gure orduko asmoa aldarrikapen horiek defendatzen jarraitzeko queremos reivindicar el futuro del concierto económico también

señor maneiro nos trae usted hoy esta moción según sus propias palabras porque responde al interés de los ciudadanos no sé de cuáles

no de los que usted representa no conozco ningún estudio sociológico ni no sociológico ni ninguna encuesta ni en el país vasco ni en álava en el que la preocupación

sea esta para esos ciudadanos no lo conozco es posible que en madrid sí para algunos

si eso es así pues bueno pues bien qué le vamos hacer aquí cada uno viene hacer el papelón que viene hacer

y que una no se la pueden no votar nadie porque quién se opone a que el cálculo del cupo sea correcto claro yo tampoco y por qué dice que usted que es incorrecto quién se opone a que el cálculo del cupo sea transparente

y que no sea solidario y luego usted coge y mete porque no queremos privilegios

por qué dice usted que hay que participar si sabe que ya participa

qué está intentando vender que no bueno pues si viene hacer ese discurso

para reformar el estado autonómico de españa lo cual me recuerda mucho a otro también que estuvo por esta cámara que también tenía un plan

pero era menos pertinaz que usted lo presentó una vez usted es que nos lo presenta cada mes y medio sí cada mes y medio otra cosa es que en fin cada periodo de sesiones pues las cosas hay que dilatarlas pero fíjese que ya empieza quien le hace caso y está cada vez mas de acuerdo con usted en que el concierto económico no vale

ya tiene socios de viaje

igualdad con uniformidad sí igualdad con uniformidad

es que los vascos tenemos más financiación y usted es incapaz

es mayor o menor que en los demás territorios se recauda más o menos es capaz de dar usted algún dato pagamos más impuestos los vascos que otros españoles porque si usted paga más si pagamos más impuestos lo lógico es que dispongamos de más dinero digo yo usted también

porque sí porque usted lo diga porque sí para qué será para las necesidades que tenemos aquí

es para unas cosas de una forma y para otras cosas es de otra entonces yo mire

pues bueno el hombre de la libreta que ha traído frases ha oído fulano ha dicho mengano ha dicho claro a usted le ha sorprendido claro el señor maroto dice que prefiere el concierto económico a la independencia oiga qué quiere que le diga

a usted qué le sorprende qué le sorprende

usted qué es usted qué defiende en ese plan que tiene

y que al nacionalismo se lo oímos también todos los días pero

usted qué es es centralista es autonomista

y yo por eso qué quiere que le diga pues ya sé a que he venido a mí no me interesa a lo que usted ha venido a mí me interesa lo de aquí que este es el parlamento de aquí para lo de aquí y a mí

sí me preocupan algunas cosas que he visto en las enmiendas de algunos grupos y en la

sobre todo del partido nacionalista vasco porque yo estoy muy de acuerdo con la señora gorospe

es de riesgo unilateral y que como usted ha dicho creo que literalmente si nos caemos españa no viene a salvarnos eso más o menos el concepto de riesgo unilateral

estamos fastidiados porque el cupo lo vamos a tener que pagar igual claro pero cuando ustedes hacen una enmienda que dice

eso qué significa que el cupo solo puede ser

con el sistema que tenemos y cuando en la enmienda transaccional

meten porque yo estoy de acuerdo con el primer punto que han planteado ustedes el parlamento vasco apoya el concierto económico como instrumento fundamental del sistema tributario dos el parlamento vasco rechaza cualquier intento de revisión unilateral muy bien de acuerdo y no pactada del cupo muy bien de acuerdo

si por el sistema de cupo nos sale a pagar más o qué pasa qué estamos revisando o estamos planteando que esto ya no es unilateral o estamos planteando que ahí va ahí va ahí va

son los españoles los que nos tienen que empezar a financiar estamos planteando pasar a ser una comunidad de régimen común pero especiales hasta aquí soy especial y a partir de aquí si las cosas me van mal que me sigan dando porque eso no es el sistema de riesgo unilateral ese no es el sistema de riesgo unilateral y al señor prieto

entonces a mí ya me empiezan a preocupar aquí lo que diga el señor maneiro no

lo que veo que ha presentado como enmienda el partido nacionalista vasco sí

yo quiero que ustedes me digan porque evidentemente no tendremos ningún problema en votar en contra del punto segundo si ustedes lo que nos están planteando

se pueda pagar más dinero al estado porque a lo mejor eso va en detrimento de nuestros ingresos porque eso no es el sistema de concierto económico y si ustedes me dicen que eso es lo que han pactado en el punto segundo nosotros votaremos porque nosotros sí que defendemos el sistema del concierto económico ese que avaló la unión europea ese que avaló la sentencia del tribunal de luxemburgo y ese que decía que el sistema que había si no había compensaciones de ese tipo
nada más y muchas gracias eskerrik asko

sí gracias presidenta ya me lo esperaba

quiero decir que no me esperaba otra cosa

sé qué es lo que ustedes defienden y efectivamente están ustedes de acuerdo en esto la izquierda la derecha los foralistas

y upyd defiende en solitario la igualdad y la solidaridad del conjunto de los ciudadanos del estado del que formamos parte

político que defiende la igualdad y la solidaridad upyd nuevamente y que tiene el mismo discurso aquí y en cualquier parte del territorio nacional decía el señor prieto que esperaba un debate fresco y de actualidad yo creo que este es un debate

lo defendemos desde el año dos mil siete pero en todo caso es un debate de actualidad basta con observar las declaraciones de diferentes formaciones políticas

dirigentes de otros partidos políticos para ver qué es lo que han venido diciendo en los últimos tiempos porque de lo que han venido diciendo y haciendo

varios regímenes que rompen esa igualdad y por eso he dicho yo y he recordado algunas palabras del señor maroto o del señor pastor o del señor lópez

un problema que existe en el país y es que no hay igualdad y por lo tanto este debate es de actualidad y en los próximos meses va a seguir siendo de actualidad es un tema candente y lo va a seguir más

y mientras no se cambia lo que proponemos en nuestro punto es que el cálculo del cupo se realice de manera correcta sin ninguna documentación hablar mal gratuitamente

cientos de páginas que han tratado el asunto en los últimos años ahí está la documentación matraca de upyd tema recurrente insistencia

no no lo hemos traído demasiadas veces a este parlamento quizás sea la primera vez que proponemos una iniciativa concreta o la segunda en cinco años la segunda decía que hay que

ideas no ideologías no paquetes formalizados ideas y una de estas ideas de upyd es la crítica al cálculo del cupo y al sistema del concierto económico porque

varios representantes políticos han venido a decir que es una estrategia no es ninguna estrategia son los principios en los que creemos no hay ninguna

sabe que no lo es en absoluto con este mismo programa y con estas mismas ideas

desde el año dos mil siete y también a las elecciones autonómicas del año dos mil nueve y a todas las demás creemos en estas ideas el sistema no es justo y hay que cambiarlo y no lo dice solo upyd lo dicen destacados miembros de sus partidos políticos

es defender la igualdad y la solidaridad y la igualdad fiscal y no existe la igualdad fiscal en españa un sistema de riesgos

cuándo nos ha perjudicado nosotros no queremos ningún sistema de riesgos queremos un sistema justo

un sistema justo e igualitario señor damborenea soy de los que piensa que defender la igualdad interesa siempre al conjunto de los ciudadanos también de los ciudadanos vascos

defender la igualdad interesa siempre al conjunto de los ciudadanos es lo mejor para todos

fin parece que hay muchas divergencias sobre el cálculo del cupo y qué es lo que realmente tenemos que pagar no parece que sea tan transparente

usted qué es yo soy lo que defiendo y el empeño en seguir defendiéndolo

yo soy lo que defiendo en este parlamento lo que he venido defendiendo durante la mañana de hoy

en este punto esto es lo qué es upyd no traten de ponernos una etiqueta qué es upyd upyd son las ideas que defiende tanto en el parlamento vasco como en otros parlamentos autonómicos o en el congreso de los diputados olvídese por lo tanto de etiquetas me preguntaba si coincido con los nacionalistas no usted

y ustedes coinciden hoy con los nacionalistas al menos en este asunto con el partido nacionalista vasco y con eh bildu ustedes coinciden con los nacionalistas

en todo caso si es un sistema tan justo tan solidario tan maravilloso por qué se niegan a conceder el concierto económico a cataluña

al resto de comunidades autónomas si es tan extraordinario si es tan justo si es tan igualitario

a cataluña o a otras comunidades autónomas claro porque es insostenible porque es inviable porque no se puede trasladar este sistema al resto de comunidades autónomas

es curioso estamos de acuerdo con que los más ricos aporten a la solidaridad estamos de acuerdo con que los países más ricos de europa sean solidarios con los más pobres pero permitimos que no ocurra lo mismo dentro del propio estado del que somos ciudadanos no estamos en absoluto de acuerdo

es evidente que existe una desigualdad fiscal y ustedes lo saben al menos tan bien como un servidor

hay una desigualdad fiscal y ciudadana evidente y nosotros creemos en la igualdad y creo que los partidos políticos que se consideran no sé si son de ámbito nacional esto deberían defenderlo sin ningún tipo de complejos defender la igualdad del conjunto de los ciudadanos del estado del que formamos parte deberían hacerlo especialmente aquellos partidos políticos nacionales y sobre todo aquellos partidos políticos que se llaman progresistas porque esto es progresismo defender la igualdad señor prieto

interna y la externa dentro del estado del que formamos parte al menos los partidos políticos nacionales deberían defender
maneiro jauna amaitzen joan mesedez esta igualdad y en todo caso termino los partidos políticos nacionales

progresistas esto es progresismo esto es defender la igualdad me quedare solo

señora presidenta señor damborenea usted hace una pregunta aquí pero de alguna forma

porque cuando contrasta la enmienda que había presentado el grupo nacionalista y la transaccional

para que donde se diga no habrá revisión se dice que no se acepta una revisión unilateral

porque la revisión del cupo está establecida así está establecida cada cierto tiempo y por tanto las partes tienen que acordar lo que

en su punto dos dice es que no vamos a aceptar que la revisión del cupo sea unilateral y que además esa unilateralidad nos lleve a una reducción de nuestra capacidad

al que sea pactado lo valoraremos en ese momento pero obviamente las partes tendrán que negociar porque efectivamente es un acuerdo entre dos partes entre

y por lo tanto tienen que llegar en la revisión a un acuerdo por tanto usted ha interpretado perfectamente cual es la enmienda transaccional y no creo que tenga ninguna dificultad ahora con esta aclaración complementaria para votarla señor maneiro es usted un pretencioso con salero hay que aceptarlo

y además lo escribe que el único partido que defiende la igualdad y la solidaridad es usted

además nos propone el sistema federal el estado federal simétrico

de hacer teoría política en el aire sin ninguna referencia en la historia sin ninguna referencia en la filosofía política en la ciencia política y la verdad es que es usted un pretencioso con salero hay que reconocerle usted tiene mucho salero

para salir aquí y decir lo que le da la gana muchas veces sin ningún rigor

la igualdad total para qué queremos la solidaridad si ya somos iguales y por qué quiere usted defender la igualdad territorial defienda la igualdad económica defienda la igualdad social que no haya ricos que no haya pobres todos exactamente igual defienda eso

no lo plantea así usted hace un batiburrillo hace un encaje hace un juego se viste con plumas ajenas y bueno

un pase torero regalándose así mismo los mejores halagos

me quiere decir un sistema federal simétrico dónde existe me quiere decir dónde existe un sistema federal simétrico porque ya sabe usted lo que es el federalismo el federalismo tiene

fundamentales básicas una la diversidad y la otra la igualdad básica hay una igualdad básica pero no hay una uniformidad

no hay un sistema federal en el que todos tengan que ser por decreto iguales esa es la uniformidad y eso no sería además un sistema democrático por lo menos no en la época que nos toca a nosotros vivir y como concebimos la libertad la democracia el pluralismo la capacidad de elegir

es posible un federalismo simétrico exactamente igual para todos eso respondería a esa sociedad plural y democrática yo sinceramente creo que tiene lo ha dicho un poco usted aquí nosotros no tenemos ideología cogemos ideas

de cualquier manera mire hipócrates decía la vida es breve

la ocasión fugaz vacilante la experiencia y difícil el juicio

la verdad señor maneiro hoy

yo sí quiero respecto a su intervención en la que nos habla de insolidaridad y desigualdad un par de apuntes

el fraude fiscal por ejemplo y no son datos míos son datos del eurostat el eurostat dice que el estado español está ocho coma cinco puntos por debajo de la media de la unión europea de la recaudación fiscal respecto al producto interior bruto mientras que

están por encima eso también tiene influencia en todo esto

los ciudadanos de hego euskal herria hemos tenido que pagar cada uno de nosotros mil novecientos euros

y de insolidaridad en su caso y que el sistema es injusto claro que es injusto es injusto porque los ciudadanos de hego euskal herria hemos tenido que pagar un ocho por ciento

que por cierto son monumentos a la sinrazón de los años

insolidaridad y eso es injusticia señor maneiro eso es insolidaridad e injusticia señor maneiro y lo demás dejémoslo y nosotros respecto al concierto nos hemos posicionado claramente lo defendemos vemos que tiene su razón de ser pero vemos que hay que ir más hacia allá no no nos vale en la situación en la que estamos no da más de sí

que se está quedando en agua de borrajas primero el déficit nos dicen que se ha acordado gatzagaetxebarria iba a ir con el uno coma cinco el consejo de ministros fijará el margen

por qué lo va a fijar si no se hubiera acordado el consejo de ministros lo fijará unilateralmente no habíamos dicho que estas cosas eran bilaterales eso también está dentro

y la última el cupazo porque esto ya no es un cupo esto es el cupazo del gobierno del pp

más del doble de lo del año pasado y ya está no

entonces si estamos hablando de bilateralidad vamos a hablar de la bilateralidad real entre iguales

eskerrik asko legebiltzarburu andrea nos pedía aclaraciones en relación con la enmienda transaccional

aclararle nuestra idea nuestra voluntad para que usted la entienda que como comparto con el señor prieto la entiende perfectamente el cupo es para pagar lo que nos toca según lo pactado bilateralmente y llevamos desde el mil novecientos ochenta y uno pagando siempre

perfectamente y defendemos como usted bien sabe el pnv

durante los treinta y tres años que no le quepa ninguna duda el concierto económico aquí y en madrid siempre nosotros pagaremos lo que nos corresponde de las cargas del estado no asumidas el índice de imputación del seis coma veinticuatro por ciento y la voluntad del punto segundo de la enmienda transaccional es que no se aceptaran revisiones unilaterales y si pone orientadas en caso negativo es porque continuamente el señor maneiro

la moción se refiere a la sobrefinanciación y en ese contexto pero desde luego

perfectamente cuál es la actitud la posición y la firmeza del pnv en relación con el concierto económico aquí y en madrid

aquí y en madrid y las facturas políticas de muchas cosas que se han conseguido para desarrollar el concierto económico

solo el partido nacionalista vasco porque es el partido que tiene que ir a madrid muchas de las cosas que aquí con consenso prácticamente con consenso

bildu defendemos el concierto esaten izan duzu lo tenemos claro pues nos alegra

que lo tienen ustedes claro porque nosotros en ese sentido sí que teníamos cierto desconcierto más que nada porque las posiciones que

defendió en esta cámara en relación con el concierto económico vigente que ahora ustedes dicen defender eran

estar continuamente escudando en una amalgama de colores de posiciones distintas que lo mismo sirven para una cosa que para otra lo que habrá que hacer es definir y nos alegramos señora pinedo de que eso sea así y

en otras muchas cosas qué defiendes ustedes porque algunos han dicho a otros han dicho

y bueno está bien le recuerdo lo que decían ohikoa denez en el debate aquí

se denominan en sentido en la esencia de bildu ohikoa denez

no creemos que sea tiempo de conciertos económicos eso es lo que ustedes decían espetxeratuak

nos alegramos no obstante hemos intentado gustándonos

de esta canción hemos intentado como usted sabe

sus dudas y contar con su voto eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea euskal talde popularraren

quiero entender que el punto segundo lo que quiere decir es que cuando se negocie la nueva ley del cupo que se tenía que haber negociado

no se negocie a la baja porque sí sino que se negocie conforme a parámetros objetivos normales y que si nos sale a pagar más será porque nos sale a pagar más y si nos sale a pagar menos será porque nos sale a pagar menos

y en ese sentido entendiendo que eso es lo que ustedes plantean en esa enmienda pues la votaremos a favor porque eso creo que es lo que les he entendido yo se también

de la libreta nos traía una moción

cuatro años sin liquidación del cupo y quería uno justo y correcto pues fíjese usted

sin liquidación del cupo porque un gobierno del partido socialista en madrid y un gobierno del partido nacionalista vasco en el país vasco no se pusieron de acuerdo

un gobierno socialista en madrid y un gobierno socialista en el país vasco no se pusieron de acuerdo

y hoy hay un gobierno nacionalista en el país vasco y un gobierno popular en madrid y está constando llegar algún tipo de acuerdo

por lo tanto este traslado de que el cupo es una

sino que es algo más complicado y que si ni gente del mismo partido se pone de acuerdo pues fíjese usted como para hacer esos apaños que usted planteando entre comillas nosotros evidentemente estamos de acuerdo en que

del concierto económico se basa en la bilaterabilidad y señora gorospe yo no le voy a negar

el partido nacionalista vasco el concierto económico pero usted no me va a decir a mí

que es evidente palmario y notorio que es que el actual concierto económico

el que rige hoy que es el que le da las mayores capacidades normativas fiscales y concertadas que ha tenido nunca en la historia del país vasco

lo aprobó un gobierno del pp con mayoría absoluta y digo con mayoría absoluta porque es que a veces hay que recordar que es que

los demás vascos también creemos en algunas cosas y cuando estamos más o menos de acuerdo

el pnv vaya a madrid a cambio de no sé qué hacer no sé qué

y digo solo este porque es que encima todavía últimamente estamos oyendo algún representante nacionalista ir explicando por ahí que si tenemos el concierto económico es porque el pp

y no voy a seguir pero vamos pero en fin reconózcanos a los demás

lo hemos defendido señor maneiro dice usted que ya se lo esperaba

claro que se esperaba lo que les íbamos a decir todos pues era evidente era evidente y me dice que es que es no podemos encasillar porque es que usted

escogen ideas hoy escogen una mañana la contraria

escogen ideas y evidentemente son incalificables ahora yo con su idea de igualdad yo claro dice esto de que todo tiene que ser igual en todas partes

de la desigualdad fiscal que no sé si usted sabe que es que de ayuntamiento a ayuntamiento da igual en que parte de españa vaya usted la fiscalidad es diferente incluso en algunos hay impuestos que en otros no existen no sé si usted lo sabe

habla tanto de los españoles y de la igualdad de los españoles nunca le he visto a usted plantear

ni a su partido pero no sé si es una idea que todavía no se les ha ocurrido y entonces no la han cogido como bandera y a lo mejor en el siguiente pleno nos lo trae usted aquí

que todo el mundo tiene que ganar lo mismo vestirse igual y a lo mejor resulta que estamos descubriendo

en el siglo veintiuno a estas alturas a un de finales de los veinte que no sabíamos que teníamos aquí

no nos lleva a ninguna parte pero la desigualdad fiscal no significa desigualdad de derechos que es en donde debería usted fijarse

y eso es lo que los gobiernos y las administraciones tienen que velar por la igualdad de derechos no por la igualdad

porque pagar todos los mismos impuestos en todas partes puede ser la mayor desigualdad